yo creo que hay que dejar claras algunas cosas porque si no puede dar lugar a malos entendidos como se ha recordado este convenio

se aprobó en el año dos mil siete para barcos mayores de eslora de veinticuatro metros y para tripulantes de más de dieciséis años

y entraría en vigor doce meses después de lo que lo ratificaran diez miembros ocho ribereños en fin a día de hoy no está en vigor

que previstos en el propio tratado que tenían que hacer y españa por qué no lo ha ratificado

ustedes mismos estaban en el gobierno vasco estaban en el gobierno de españa

este convenio si se aplicara en españa los trabajadores del mar españoles perderían derechos o ganarían derechos

a lo mejor saldrían perjudicados porque los derechos que tienen son superiores a los que vienen en este convenio entonces

por nadie para que esto esta ratificación se produjera

cuando no han gobernado tampoco lo han planteado en el congreso de los diputados y lo que me sorprende es que lo plantee usted justo ahora que las cortes están disueltas

de verdad hay tanto interés en el partido socialista de euskadi

desde el año dos mil siete estamos a finales del dos mil quince y lo traen justo cuando las cortes están disueltas no deja de tener su cosa

tímidos avances depende porque usted sabe que la patronal española

usted sabe que los sindicatos españoles están a favor de la ratificación usted sabe además que como casualmente el presidente de los empresarios

los sindicalistas europeos para que se aplicara en la unión europea y solicitaron a la comisión europea en el año dos mil trece

mediante una decisión del consejo conforme al tratado de funcionamiento de la unión europea y en dos mil catorce es decir la parte social empresarios y trabajadores estaban de acuerdo y en dos mil catorce acudieron al defensor del pueblo europeo porque ni les contestaban desde

algunos sabrán por qué en la unión europea

y hay una encuesta que hizo la propia oit en el año dos mil trece a los agentes implicados en españa para ver esto por qué no avanzaba

quiénes no contestaron a esa encuesta que se hizo de los que se pidió su opinión el ministerio de asuntos exteriores porque dijo que esperaba saber la respuesta de los otros ministerios implicados que al menos había otros dos

y el sindicato ela que también el sabrá porque no contesto a la encuesta que hizo la oit y quiénes estaban a favor de la ratificación

el director general de la marina mercante el instituto social de la marina la secretaría general de pesca

comisiones cepesca todos

que decía que no hacía falta ratificarlo porque no aportaba nada porque la legislación que teníamos en españa era muy superior

no iban a quedar pescadores a los que aplicarle el sistema más o menos fue lo que plantearon los gallegos

y que decía ugt que hoy por hoy las condiciones contempladas en los buques españoles están por encima del ciento ochenta y ocho y la única viabilidad o posibilidad es que se amplíe a trabajadores extranjeros

y cepesca decía que los estándares españoles superan ampliamente los estándares del ciento ochenta y ocho es decir todos están de acuerdo

entre otras cosas porque todos están de acuerdo en que no tienen que hacer gran cosa por qué porque usted lo sabe que españa en estos momentos y en esta materia probablemente sea

que están y fíjese usted si la patronal española está de acuerdo que no hace ni cinco meses una empresa

ha firmado un convenio colectivo de alcance mundial y global

y la única virtualidad que tiene es que amplían los derechos de los trabajadores españoles a trabajadores extranjeros es decir digo para que nos coloquemos y ubiquemos todos en dónde estamos y de qué estamos hablando

el gran motivo por el que todos están de acuerdo que usted lo ha señalado es para intentar evitar el dumping social es decir si los buques españoles

que tienen menos costes laborales lo que pasa es que también todos ellos reconocen que en el fondo claro los buques de esos países y esos no aplican por mucho que ratifiquen ese convenio no lo aplican o no velan para que se cumpla

otro motivo por el que nosotros sí estamos de acuerdo con ellos es que aunque enespaña no tuviera ningún efecto sí sería uno de los países que pudiera dar ejemplo a todos los demás y que si se suman más países y al final llegamos al de los ocho rivereños pueda entrar en vigor

vamos a votar a favor como no podía ser de otra manera si lo que le preocupaba era la unanimidad no va a ser por nosotros que evidentemente
estamos a favor de ratificar este convenio eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz

más de lo que quizá en un momento determinado el grupo socialista preveía pero está muy bien que profundicemos si así lo queremos en el debate

son los países que ya han ratificado el convenio sin comentarios francia antes que nosotros coincido con el

último interviniente con el grupo popular en que

la mayor flota de la unión europea una de las mayores flotas del mundo

y los otros no y la ratificación de este convenio no repercute ni siquiera en nuestra flota usted acaba de nombrar un acuerdo efectivamente de itf debido a una denuncia de un pescador keniano

se le aplicaban trescientos dólares al mes de convenio como convenio ocho meses de estancia a bordo de los buques

a que un grupo que apenas utiliza pabellón español es decir que tiene sus barcos en terceros países que ese grupo

yo sí quiero dar un toque en relación de por qué puedo hablar con cierta

del convenio marítimo en este caso el año dos mil seis como representante de los trabajadores españoles en la oit

ni incluso al partido actual en el gobierno aunque esté en funciones porque sé que el trámite necesario son al menos siete u ocho años cada vez que

y va cumpliendo los plazos necesarios para que lleguen a los países y realmente después

es así y por eso cualquier tema decir oiga mire perdóneme estoy de acuerdo con usted en algo fíjese

de que en este momento no haya gobierno cuando el gobierno socialista esté gobernando a partir de enero ratificaremos evidentemente este convenio ciento ochenta y ocho

voy a terminar con la necesidad de negociación colectiva y totalmente de acuerdo con las palabras

no nos hagamos trampas no en nuestros barcos incluso con pabellón

no lo tienen no son de nacionalidad española no lo son son de terceros países algunos dicen de color negros de todo el mundo de todas las procedencias del mundo indonesios incluso y en europa pasa lo mismo veamos esta realidad les atañe o no el que pidamos o podamos tener y decir

sí no dibujemos realmente algo que no es así atañe incluso a trabajadores que están trabajando en flota

hasta euskadi y esto es importante conocerlo y voy a terminar no hay absolutamente ninguna pretensión de hablar de este tema porque sí

que el mayor avance y en la moción se dice es normalizar aquí también un sector que no está normalizado y eso se hace desde la negociación colectiva porque es la negociación colectiva la que además puede adoptar medidas de prevención en los barcos

hasta ahora solamente se hacen fuera de los barcos por ejemplo en euskadi con

un buen trabajo por cierto y no es más que ese deseo de normalización laboral también en nuestros barcos las que nos mueve realmente

insisto todos ustedes digan que sí a la ratificación de este convenio y que sí a que como decía el otro día la consejera

nos traerá la normalización sectorial y será además

en el mundo de la pesca eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna

congratularme de que seguramente consigamos la unanimidad

muy de acuerdo en todo lo que se va a aprobar hoy y simplemente me ha quedado una duda de una pregunta que he hecho y no se ha respondido por qué hoy se propone esto y no se propuso cuando el partido socialista gestionaba la pesca en euskadi y gestionaba
la pesca en el estado español muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

sí muchas gracias señora presidenta efectivamente los trámites son largos el convenio es del año dos mil siete pero cuando los trámites son tan largos lo lógico es empezar desde el principio

como ha ocurrido en españa que es a partir del dos mil trece en fin gobernando el partido popular y cuando el partido socialista dejó de gobernar en españa y en el país vasco
cuando esos trámites se han empezado a dar nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

han convertido en objetivo principal casi único de la política presupuestaria cuestiones instrumentales como el control del déficit y la deuda pública de manera

que las pensiones la sanidad o la educación en definitiva han supeditado el ser un agente activo de la economía a ser un mero administrador

la sacralización de los límites del déficit y deuda pública consecuencia directa de poner

de la crisis económica en el sector público algo que se ha demostrado del todo erróneo llevó en el estado a la modificación del artículo ciento treinta y cinco de la constitución modificación que hicieron partido socialista y partido popular en un mes en pleno agosto sin consenso social y al margen de cualquier consulta ciudadana

el partido socialista obrero español critica la modificación del artículo ciento treinta y cinco de la constitución no solo fue un error un error basado en una confección

y la economía sino un ataque directo al bienestar de la sociedad en aquellos días destacados dirigentes estatales dijeron que la reforma del artículo treinta y cinco de la constitución ponía a salvo elestado del bienestar y las políticas sociales y la realidad ha sido

recortes de derechos recentralización e involución social konstituzioaren aldaketa hori

ha supuesto no solo una reducción de los márgenes de las comunidades autónomas para adoptar una política presupuestaria propia en el marco de su autonomía financiera sino también un condicionamiento de sus decisiones sobre las materias concretas de su competencia

puede mediante la imposición de objetivos especialmente rigurosos condicionar el presupuesto y las propias políticas sectoriales de las comunidades y la comunidad autónoma vasca no es una excepción estos últimos tiempos venimos oyendo defensas cerradas del concierto económico de la autonomía financiera

un claro ejemplo del ninguneo de esa tan alabada autonomía financiera porque quién sino el gobierno del estado ha fijado los límites de déficit

la rebuscada regla del gasto que impide a las administraciones públicas gastar por encima de la tasa de referencia del crecimiento del pib a medio plazo que determina el propio ministerio

la ley de estabilidad financiera es un ataque frontal a nuestra autonomía financiera por mor de esta ley y la acción de este gobierno nos encontramos ante una política presupuestaria

de nuestra sociedad egonkortasun legearen aplikazioan

muchas gracias señora presidenta yo supongo que a la señora pinedo no le sorprenderá que le digamos que no somos partidarios de lo que nos ha propuesto

quiero decirle que hay algunas contradicciones en su discurso primero los requisitos para entrar en el euro no fueron liberales

fueron los que establecieron los países que querían hacer una moneda única para los países que quisieran entrar en esa moneda única

había mucho gobierno socialdemócrata en aquella época también en esta pero es que lo de los principios liberales como discurso queda muy bien pero la realidad

y por qué se pusieron esos criterios porque cuando alguien quiere hacer algo en el que le afecta lo que hacen los demás y le puede perjudicar

para que alguien no estropee a todos los demás el club y cuál es la siguiente normativa que existe en esto pues mire algo muy fácil es decir nadie está obligado a entrar en el club

puede salirse usted no quiere cumplir las reglas del club se sale entonces pero usted no nos haga este discurso díganos que ustedes plantean que salgamos del euro hay otros países que están planteando igual salir de la unión europea que no es obligatorio estar lo que pasa es que hay muchos países a la cola que quieren entrar yo no sé debe ser tan malo tan malo

que casi todo el mundo quiere entrar usted critica las reglas de juego que los países del euro se dieron a sí mismos para poder entrar en el euro y critica el déficit y usted lo critica todo y nos dice que aquí nos hemos cargado el estado de bienestar social

y yo le tendré que decir que precisamente ha sido todo lo contrario ha sido todo lo contrario y no voy a recordarle que solo hace cuatro años

que eso sí que era cargarse el estado de bienestar social

como ha ocurrido en otros países como grecia que casualmente sí que se han cargado su estado de bienestar social por qué

porque no solo incumplieron todas las normas es que encima mintieron

y la culpa es de los demás no ahora quieren seguir en el club quieren seguir en el club no se van del club

que los que no están quieren entrar y los que están no quieren salir

claro pues oiga si usted quiere estar en un club en este caso el del euro

lo que haría falta aquí es un poco de claridad y decirles a los ciudadanos lo que de verdad estamos planteando

no cumplir los requisitos del euro díganlo claramente

porque como usted comprenderá los demás países no van a estar pendiente de si a bildu le gusta este requisito o le gusta otro

curiosamente un debate que no existe en el resto de europa con los cumplimientos de los requisitos del euro todo el mundo dice que hay que cumplirlos otra cosa es que unos hagan más trampas y otros menos

nadie plantea no cumplirlos usted dice y la comunidad autónoma vamos a

para garantizar el cumplimiento de las leyes como en todos los estados democráticos y en esos se incluyen los tratados internacionales

y desde luego todas las administraciones ya sean comunidades autónomas ya sean ayuntamientos ya sean diputaciones evidentemente esa es la obligación del estado y ni no planteen ustedes donde corresponde que nos salgamos del euro a ver qué mayorías obtienen claro no sí sí claro dice usted el tamaño de nuestra deuda no es tanta podemos a ver el tamaño de nuestra el tamaño de la deuda del gobierno vasco

los vascos y a ver si sumamos de verdad la deuda del gobierno vasco más de las sociedades al cincuenta por ciento que no computan aquí ni allí luego sumamos las de las diputaciones luego sumamos la deuda de los ayuntamientos y luego sumamos el porcentaje que tenemos de la deuda de españa

de la deuda de los vascos pero de la de verdad que parece que aquí nadie está dispuesto a hacer esa cuenta

claro y luego cuando aparecen comunidades autónomas como la catalana que de repente aflora otro déficit

es el estado español el que incumple los criterios del déficit claro claro entonces qué tiene que hacer evidentemente que todo el mundo cumpla las normas

y por eso entramos y por eso pedimos incorporarnos al euro y b las que nosotros mismos nos hemos dado y eso sí que es democrático y eso sí que es

el que los pensionistas en estos cuatro años no solo no hayan visto recortados sus ingresos sino que lo han visto incrementados pregúnteles en grecia a ver qué ha ocurrido

a ver qué ha ocurrido o pregunte en otros países queincumplieron las normas y luego pidieron en rescate qué les ha ocurrido aquí por ejemplo eso no nos ha ocurrido

en que nos hemos cargado el estado de bienestar social no creo que encuentre a mucha gente

que él ha sufrido eso sino precisamente lo contrario y eso ha sido como usted decía

por llevar una política presupuestaria equilibrada y sostenible eskerrik asko damborenea jauna mistoa

sí gracias presidenta vamos a analizar qué es exactamente lo que nos propone

propuestas concretas por un lado eh bildu lo que nos propone es que nos manifestemos en contra de la modificación del artículo ciento treinta y cinco

y solicitemos su derogación nos propone también que defendamos la eliminación de la obligatoriedad de la regla de gasto establecida en la ley de estabilidad presupuestaria además del de cumplimiento de los objetivos de déficit y endeudamiento y

y desarrollar los presupuestos vascos vayamos por partes yo estoy de acuerdo en alguna de las cosas que se señalan en la justificación de la iniciativa

y de los presupuestos que les sirven de soporte son el fomento de la cohesión social

y el establecimiento de la orientación y las bases para un desarrollo económico equilibrado estoy de acuerdo con esto que se señala en la justificación

se señala que los presupuestos han tenido como objetivo principal cuadrar las cuentas y controlar rigurosamente la deuda y el déficit efectivamente desgraciadamente esto ha sido

del artículo ciento treinta y cinco de la constitución española nosotros votamos en contra de aquella modificación tanto por la forma en que se perpetró como por el fondo fue una reforma llevada a cabo con agostidad y alevosía

sin debate público ni acuerdo con el resto de fuerzas políticas sin referéndum

de la ciudadanía hoy esto lo reconoce incluso el propio partido socialista qué era lo que se pretendía

a través de la modificación de ese artículo ciento treinta y cinco la consagración del principio de estabilidad presupuestaria la supeditación de la política de deuda a las decisiones europeas la prioridad absoluta en los presupuestos del estado para el pago de la deuda cuyas condiciones no podrían ser renegociadas y límites de deuda por ley que solo podrán incumplirse en caso de catástrofe naturales recesión económica o situaciones de

aquella reforma la votaron de la mano el partido popular y el partido socialista obrero español y hubo únicamente cinco diputados que votaron en contra de aquella iniciativa porque hubo algún grupo que prefirió salirse de la cámara

figuraba la única representante de upyd y también dos dignos socialistas que decidieron romper el voto del partido socialista en relación a esta cuestión por qué votamos en contra por lo tanto tanto por la forma

el artículo ciento treinta y cinco tal y como quedó reformado lo que hace es maniatar a los gobiernos e impedir que se pueda utilizar ese recurso para hacer política económica

se decretaba que solo hay una política económica posible la que sacrifica todo al pago de la deuda por lo tanto tanto por la forma como por el fondo votamos en contra de aquella reforma sin embargo hay que decir que aquella reforma tuvo

puso algo de manifiesto más allá de los efectos que produjo la reforma aquella

aquel hermanamiento deficitario tuvo la virtud de demostrar a quien todavía no estuviera convencido de que

es curioso porque el partido popular y el partido socialista no decidieron reformar la constitución española para garantizar la igualdad del valor del voto

el entramado institucional o el modelo territorial del estado sino que la modificaron para limitar el margen de maniobra de los gobiernos democráticamente elegidos y ciertamente fue un absoluto escándalo como lo que vino a continuación más paro

más injusticia y más corrupción los españoles tuvieron por fin que admitir que ambos partidos eran las dos caras de un régimen dedicado solo por lo tanto sí tuvo esa virtud se puso de manifiesto a finales del año dos mil once que efectivamente el partido popular y el partido socialista eran

lo mismo y por todo ello upyd votó en contra de la reforma por el fondo como por las formas empleadas para llevar a cabo esa reforma

a la estabilidad presupuestaria a la deuda al endeudamiento al déficit a la sostenibilidad presupuestaria o al saneamiento

posiciones posibles a mantener hoy tanto en euskadi como en españa como sobre todo en el conjunto de la unión europea hay digamos tres posiciones

por un lado están los apologetas de la austeridad sin límites y los recortadores sociales por otro lado están los populistas

es decir los que proponen desandar lo andado abandonar el euro volver al estado nación o aislarnos del mundo y finalmente está la tercera europa

de la austeridad sin límites y frente a los populistas surgidos de aquellos o estamos los que queremos defender esa tercera europa los que defendemos una europa de ciudadanos libres e iguales y los que defendemos políticas económicas

de los ciudadanos y su bienestar lo que queremos seguir estando

pero queremos mejorar en lo posible ese club

las reglas de ese club los que defendemos una política económica humana que tenga como objetivo fundamental defender los servicios públicos esenciales y los intereses de los ciudadanos pero más ideas y argumentos en relación a este debate ciertamente interesante el incremento del endeudamiento y del déficit repercuten

por lo tanto es bueno tener controlados y que exista estabilidad presupuestaria es bueno tener controlado tanto al endeudamiento

nosotros somos partidarios de tener las cuentas públicas saneadas y creemos que quien proponga lo contrario está ofreciendo pan para hoy y hambre para mañana

ahora sigo con la explicación ya verá usted lo va a entender una cosa

y otra bien distinta es la forma de alcanzarlo una forma es alcanzarlo vía recortes sociales y reducción del estado de bienestar

tratar de vender la idea de que el simple establecimiento de un objetivo de déficit es la razón por la cual los gobiernos impulsan recortes sociales es dar una baza argumental a los recortadores sociales que son quienes

a decirnos impulsamos recortes sociales porque europa nos obliga y porque tenemos que cumplir el objetivo de déficit cosa que es absolutamente falsa

el objetivo de déficit se puede alcanzar a través del impulso de recortes sociales o de recortar en educación y sanidad

millónes de euros anuales una forma de desaprobar copagos de todo tipo y otra fusionar municipios con lo cual nos ahorraríamos dieciséis mil millónes de euros anuales

y el estado del bienestar y otra reformar las instituciones acabar con las duplicidades y corregir las ineficiencias lo cual en el conjunto de españa

una forma es impulsar políticas para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres y otra enfrentar la corrupción lo cual nos supondría un ahorro de cuarenta mil millónes de euros al año o luchar contra el fraude fiscal

son dos formas distintas de hacer política una forma reaccionaria la de los recortadores sociales y una forma progresista y para euskadi evidentemente valen

creo que están confundiendo el objetivo de déficit que es una cosa por lo tanto con la forma de alcanzarlo que es otra cosa bien distinta en todo caso nosotros pensamos que hay que cumplir

vigente por lo tanto el objetivo efectivamente es algo que se señala en la propia justificación los objetivos principales de las políticas públicas y de los presupuestos que les sirven de soporte

y el establecimiento de la orientación y las bases para un desarrollo económico equilibrado y con el objetivo de alcanzar esos objetivos nosotros hemos presentado nuestra enmienda de totalidad manifestarnos evidentemente en contra de la modificación del artículo ciento treinta y cinco perpetrado por el partido popular y por el partido socialista

y por otro lado evidentemente considerar absolutamente indispensable aprobar unos presupuestos respetuosos con la legalidad vigente y sin recortes sociales

esto es lo que básicamente defendemos y esto es lo que perfectamente puede hacerse si existe voluntad política esa creo que es en definitiva
la tercera europa que nosotros defendemos gracias eskerrik asko maneiro jauna

presidenta señorías este es un debate que tiene interés que está de actualidad que lo va a seguir estando

un tiempo adelantado y una cámara equivocada porque efectivamente la modificación de la constitución

la política de déficit la política de estabilidad presupuestaria son políticas de marco

y también de marco europeo y ciertamente son políticas sobre las que hay posiciones políticas ya muy enfrentadas entre otras circunstancias porque han demostrado a lo largo de este tiempo

dónde están los errores dónde están las equivocaciones o dónde está la repercusión negativa de esas políticas a lo que puede ser el interés público el interés ciudadano el interés de la mayoría

ya lo saben ustedes bien este fin de semana celebra una conferencia esa conferencia acordará su programa electoral

a los ciudadanos pretende entrar en este tipo de

económica de nuestro país y como ya se ha anunciado en más de una ocasión entre otras cosas pretendemos corregir el artículo ciento treinta y cinco de la constitución que desde hace mucho tiempo

ya calificó como un error el haber hecho aquella modificación en su día un error el que tenemos voluntad de hacer correcciones obviamente en estos momentos no se da ni la correlación de fuerzas políticas en el país ni las condiciones por el momento de la política para ello

y disueltas las cámaras y en segundo lugar porque la legislatura que nos ha traído hasta aquí es una legislatura de mayoría absoluta del partido popular

no tenía una posibilidadde ejecución práctica en la política parlamentaria en la política de las cortes generales pero tenemos la voluntad con otra mayoría que tenemos el interés de liderar y que así

a la ciudadanía española hacer algunas correcciones sobre la política económica y presupuestaria que se está haciendo en este país y como digo una de ellas es la modificación del artículo ciento treinta y cinco de la constitución evidentemente desde una perspectiva socialista que se garantice la educación que se garantice la sanidad que se garantice las pensiones es una prioridad de una política de bien común

socialista es una prioridad de una política de interés ciudadano de interés colectivo y esto está cercenado mediatizado en cierto modo por lo que significa la modificación que se hizo en su día

de la constitución de la misma forma que una política de déficit una política

en la austeridad que en su día se impuso desde la unión europea y que aquí se ha adaptado de una forma con la que nosotros hemos tenido una posición crítica

primero peleando en la unión europea esa política de déficit abriendo los márgenes viendo esos márgenes cómo se desarrollan y después también en este país distribuyendo esos márgenes que están relacionados con la capacidad de endeudamiento y por lo tanto con la capacidad de financiación de los ciudadanos

de los ciudadanos bien en eso estamos en eso estamos los socialistas eso forma parte en estos momentos de nuestros objetivos políticos

y claro que en españa se necesita otra política económica otra política social otra política de déficit otra política de

como prioridad el interés del ciudadano y no otros intereses minoritarios pero como decía al principio esto pertenece

de otra cámara aquella que se formará a partir del veinte de noviembre corresponde a otro liderazgo político diferente al actual al que aspiramos nosotros y por eso decía que aunque el debate es interesante la cámara están equivocados no es este el momento no es aquí donde podemos hacer esas modificaciones no es aquí donde podemos lograr esas políticas

si así lo quiere la ciudadanía española como consecuencia de un cambio profundo que se tiene que producir en ese marco electoral por eso más allá de apreciar un interés en la filosofía de la iniciativa que

algunos elementos de coincidencia con ella no creemos que esta cámara con su aprobación aportaría absolutamente nada y por eso nosotros

aprobación de este planteamiento que se hace que además en su último punto las conclusiones las deriva a una política

que no es al que tiene que ir dirigido los dos puntos primeros porque no es algo que se pueda

de los presupuestos de la comunidad autónoma sino en todo caso en el marco de los presupuestos

un interés de participación de este parlamento en esos puntos pero sin embargo la conclusión a la que lo lleva que es el punto tercero

no guardan relación y por eso tampoco consideramos que es una iniciativa desde el punto de vista técnico desde el punto de vista del método que se ha usado

acertado esta es la posición del grupo socialistas vascos muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

la norma foral doce barra dos mil doce de aprobación de los presupuestos del territorio histórico de gipuzkoa del dos mil trece decía exactamente leo la responsabilidad financiera y presupuestaria exige continuar la senda marcada por el objetivo de mantener las cuentas públicas bajo control

los objetivos marcados por la unión europea para dos mil veinte cumplir los objetivos marcados por la unión europea para el dos mil veinte eso es lo que ustedes ponían

principios de disciplina presupuestaria es decir igual igual que el gobierno vasco y que el resto de instituciones gobernadas por el pnv

y es que la diputación foral de gipuzkoa cuando gobernaba fue el primer ejecutivo territorial que aprobó un texto

expresa un texto normativo con la voluntad expresa de disciplinar a todos los municipios de su territorio para que cumplieran estrictamente y rigurosamente

en la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las

coherente con la normativa europea y conforme con lo establecido por la ley orgánica dos barra dos mil doce le suena qué pone usted en el texto y qué es lo que ustedes han hecho pues eso es lo que ustedes dicen pero es que además usted en su discurso hablaba de la política neoliberal

azken datuen arabera recursos financieros de las administraciones públicas de la comunidad autónoma de euskadi

ahorro neto y capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas

con que el gobierno vasco en el dos mil trece para poder financiar todo el gasto social educación y todo el modelo vasco de protección social recurrió

en riesgo la sostenibilidad financiera de los presupuestos de setecientos cincuenta millónes le voy a dar el dato de gipuzkoa ciento ocho millónes de superávit ciento ocho millónes de superávit me quiere decir usted cuál de los dos ejemplos es un ejemplo de política neoliberal qué denuncia usted cuando está diciendo

zer ipintzen duzu indarrean zer baloratzen duzu hau durante el año dos mil trece se ha procedido a la amortización de la totalidad de la deuda eso es un valor para usted ahora si gobierna el pnv es política neoliberal

y dice usted también los ingresos corrientes cubren los gastos corrientes y se prevé que el ahorro neto aumente así ahorro neto

no se prevén prestamos zintzoa izan behar da politikan

beharrizanak asetzeko aukerak arriskuan jarri hay una cosa que tenemos clara que no podemos recurrir

y así hipotecar las posibilidades que generaciones futuras tendrán de poder satisfacer también sus necesidades eskerrik asko

del resto de los grupos tienen un resumen que la realidad no te estropee un gran titular

se ha basado en conjeturas sobre lo que yo he venido a plantear aquí excepto el señor maneiro en algunos apartados luego ya lo hablaremos porque los demás

lo que ustedes hubieran querido escuchar para

literalmente a eh bildu mire señora

la suya y la de su partido porque yo no he dicho en ningún momento lo que usted ha venido a decir aquí yo no he dicho en ningún momento

vamos a romper vamos a destruir ni vamos a hacer una insumisión presupuestaria

sus congresistas en madrid yo aquí hoy no lo he dicho y nada más lejos de la realidad señora gorospe una vez más ha optado por el recurso fácil de que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en las instituciones y además es que ha personalizado en mí ha personalizado en un presupuesto que yo gestioné estando en un ayuntamiento y evidentemente

quitaba la deuda que su partido se había dedicado a dejar de ejercicios anteriores pero no por ello hice ni un solo recorte ni uno ni en políticas sociales ni en ninguna otra política de necesidad en mi pueblo es más fuimos nosotros los que pusimos las ayudas a las familias con necesidades sociales para pagar impuestos locales cosa que ustedes jamás hicieron porque siempre lo ponían en el presupuesto pero siempre se les olvidaba hacer

así que hipocresía la suya y la de su partido señora usted otra vez y otra vez lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer que están en contra de la ley de estabilidad abstención en el congreso de los diputados señora gorospe y que ustedes tienen las bueno pues esas prioridades que tanto les gusta alardear pero es que insisto palabras textuales del lehendakari

zerbitzuak bermatzea este es la cuestión hay que poner por delante los servicios y lo otro

instrumentos instrumentos y ustedes convierten los instrumentos en fines y se separan de los fines y no echen a los demás lo que son ustedes los únicos culpables de hacerlo señor prieto la verdad es que hoy yo no sé si he venido al parlamento de

electoral del partido socialista que entiendo que cualquier momento es bueno para meter la cuña señor prieto

tanto ustedes como ustedes el papelón del día van a votar en contra de la propuesta de eh bildu se van a posicionar a favor por lo tanto del artículo ciento treinta y cinco de la constitución

porque usted ha dicho que el psoe va a derogar es que fue lo que dijo el señor sánchez ergo por qué el partido socialista de euskadi no se posiciona en contra de la modificación del ciento treinta y cinco de la constitución porque hace bien poco sus compañeros de navarra lo hicieron y también era el parlamento navarro y no el congreso de los diputados y no les pareció que era

erróneo y una cámara equivocada lo hicieron en el parlamento de navarra sus compañeros del partido socialista y otro tanto a la señora gorospe sus compañeros navarros también lo hicieron hace poco en el parlamento navarro pero al parecer la comunidad autónoma es la arcadia prometida y no hay que hacer este tipo de aclaraciones de verdad yo

a votar ustedes en contra porque según ustedes eh bildu pues bueno no tenemos

claro el problema es quién lee y cómo interpreta porque la interpretación para mí es muy clara y lo he explicado en mi primera intervención como he dicho antes insisto que la realidad no te estropee un buen titular y eso es lo que les ha pasado hoy a ustedes eso es lo que les ha pasado votarán en contra de esto según ustedes le darán un zaplastako a eh bildu al parecer que es

pero en realidad ustedes le están dando un golpe a la sociedad a los derechos sociales a un verdadero desarrollo de un estado del bienestar a una sociedad

señora presidenta no quisiera entrometerme

de las dos representantes nacionalistas que han intervenido antes pero yo creo que un poco ambas tienen y digo un poco porque si la señora pinedo le hemos entendido mal y ella no plantea la salida del euro

partiré de la base de que entonces todos tienen que cumplir los criterios de déficit verdad por lo tanto en fin

se contradice con la finalidad que usted propone y lo mismo podría decir de la representante nacionalista que está también en contra de esa normativa pero que también está a favor de la normativa donde está la unión europea porque queremos seguir en el euro por lo tanto yo casi me voy a congratular de que estemos todos de acuerdo en seguir en el euro que era lo que nosotros planteábamos en esta enmienda

en que el grupo nacionalista vasco eh bildu el partido socialista el señor maneiro

en esta actuación y el partido popular estamos todos de acuerdo en seguir en el euro y por lo tanto tengo que deducir que estamos de acuerdo en cumplir los requisitos para seguir en el euro

sí que hay bastante de hipocresía en algunos discursos perdón en casi todos los discursos que he oído no solo en las de las dos representantes bueno señor prieto a esta cámara no le compete

ustedes han traído en el primer turno una proposición de ley que modifique el estatuto la constitución y el concierto económico

en fin por estas pequeñeces que no ocurren a todos con las contradicciones que tenemos otra cosa es que a usted tampoco le guste el debate

en la situación en la que está el partido socialista en esta materia vamos a ver tener más deudas o menos no es de derechas o de izquierdas que alguien quiebre una empresa o un estado no es de derechas o izquierdas

eso depende de los ingresos y de lo buen o mal gestor que ese sea de derechas

porque sí sé la pedazo deuda que le dejaron estos señores en la diputación de gipuzkoa

es mejor no pagar intereses a los bancos y destinar el dinero

para eso es fundamental no tener que pagar intereses ni amortizar deudas pero usted hoy nos ha venido a decir que no que hay que hacer lo contrario

pago de la deuda mil ciento noventa emitimos deuda

que ya vendrá alguien a pagarla claro esto es una buena gestión pues no yo entiendo que no no sé los demás lo que entienden no sé si es de derechas o de izquierdas porque he visto a gente de derechas por todo el mundo hacer eso y a gente de izquierdas hacerlo

un problema de buenos gestores o malos gestores de manirrotos o no manirrotos de decidir en qué queremos gastar el dinero de los ciudadanos

a veces es necesario pedir un prestamo y pagar intereses pero lo normal lo normal cualquier persona normal

no se plantea estas cosas nadie quiere tener deudas

no es bueno tener deudas nadie quiere pagar a los bancos dinero o por lo menos yo no conozco a nadie que vaya por la calle diciendo quiero pagar más dinero a los bancos quiero tener más deudas

una regla bastante normal de sentido común

cuando gestiona su dinero su vida su patrimonio

las cuentas públicas son más o menos lo mismo y yo señor maneiro para cambiar las reglas del juego claro cambiar las reglas de juego oiga según llegamos al gobierno lo primero que hizo el señor mariano rajoy fue plantear eso y acelerar la unión bancaria y la armonización fiscal porque esas son las reglas del juego que hay que cambiar para que europa sea más europa porque nosotros sí queremos más europa y en eso nos diferenciamos de los nacionalistas es que nos dicen desde allí lo que tenemos que hacer aquí no nos dejan hacer oiga pues se sale de europa y hágase usted lo que le dé la gana

y nosotros queremos estar en europa y en el euro y además más europa y más competencias en europa y más armonización de todo tipo en europa pues esas son las medidas que mariano rajoy y el partido popular han planteado en europa y que poco a poco

sí gracias señora presidenta la señora pinedo me iba a responder al final de su intervención pero se le ha olvidado

digamos resumir un poco mi primera intervención para que queden lo que nosotros consideramos que son dos ideas que pensamos que son muy importantes porque este es un

pedagogía política económica o democrática que no sirva únicamente para en fin atacar al resto de grupos en relación a qué es lo que han hecho o lo que han venido haciendo en los últimos tiempos por explicar brevemente cuál es nuestra posición nosotros y somos muy críticos en relación a la modificación del artículo ciento treinta y cinco de la constitución española por las razones que he explicado tanto por el fondo como por la forma dicho esto evidentemente pensamos que hay que cumplir la legalidad vigente y evidentemente también hay que cumplir con el objetivo de déficit

pensamos que cuando la deuda está desbocada o el déficit también va mal o se incrementa pues eso es malo para el conjunto de la ciudadanía y por lo tanto

políticas económicas que vayan en la línea de tratar de reducir la deuda el endeudamiento y el déficit público y esto creo que es perfectamente

de grupos parlamentarios de esta cámara es bueno por lo tanto que las cuentas públicas estén saneadas esto tendrá una repercusión después positiva en relación al mantenimiento o al fortalecimiento del estado del bienestar qué es de derechas o qué es de izquierdas

o de izquierdas pero yo creo que más o menos puedo saber qué es aquello que es reaccionario

es que para alcanzar ese objetivo de déficit se pueden tomar una serie de decisiones

y hay una serie de decisiones que son profundamente injustas y reaccionarias que son las que durante los últimos tiempos los diferentes gobiernos han venido aplicando y hay otras opciones progresistas para tratar de cumplir el objetivo de déficit y lo he explicado

en el ámbito educativo o en el ámbito sanitario que proceder a una reforma del estado autonómico para reducir duplicidades o ineficiencias no es lo mismo acabar con el gasto social implantar copagos que reducir o suprimir las diputaciones provinciales los entes superfluos luchar más contra el fraude fiscal o luchar más contra la corrupción son medidas distintas por lo tanto las políticas progresistas serán aquellas que van en la línea de impulsar esas medidas

las que harán posible que cumplamos el objetivo del déficit y a la vez salvemos y no solamente salvemos sino que podamos fortalecer el estado de bienestar

señora pinedo una cosa que creo que es muy importante que usted tenga en cuenta

de que el cumplimiento del objetivo del déficit obliga a impulsar recortes es un grave error argumental porque de esta forma usted está dando a los recortadores sociales para seguir impulsando recortes sociales porque es básicamente lo que han venido a decir durante los últimos años tanto el gobierno del pp

no queda otra que impulsar recortes sociales si usted no ha dicho eso mejor

no no es necesario impulsar recortes sociales menos en la euskadi de hoy

y mucho menos en la españa de hoy con el gasto superfluo que sigue existiendo y esa idea creo que es la más importante que debemos lanzar y que yo quería lanzar dicho esto no votaremos a favor de la iniciativa original

sí señora presidenta un par de consideraciones una señor damborenea

afirme que este parlamento no es competente para hacer el debate político que considere oportuno otra cosa es

a no aprobar una propuesta que hace el grupo bildu

porque bildu plantea que se modifique el artículo ciento treinta y cinco o se derogue

plantea que no se atenga el presupuesto a los criterios de estabilidad presupuestaria endeudamiento y déficit

del estado español y que eso se aplique a los presupuestos de la comunidad autónoma algo que así definido es absolutamente imposible y usted lo sabe

aquí es que no le acompañamos en el planteamiento concreto que hace

nos parece adecuado y además nos permite como dice

política que vamos a hacer este fin de semana de la misma forma que a usted y a su grupo le permite cualquier intervención

nos enfadamos como usted que se pone aquí como una fiera cada vez que le llevamos un poquito la contraria

de relajación que tampoco pasa nada un poquito de tranquilidad

nosotros queremos reformar el artículo ciento treinta y cinco de la constitución porque copiando unas palabras del señor maneiro pero dándole la vuelta si

se hubiera modificado en ese tiempo para garantizar

o sea fíjese que muchas veces los planteamientos políticos dependiendo del contenido te pueden llevar a que puedas estar de acuerdo pero no fue así no fue así yo estoy absolutamente convencido que quien impulsó esa reforma lo hizo pensando salvaguardar un bien mayor

interés de que la política de austeridad de la unión europea que de alguna forma influyó en aquella decisión fuera un fracaso como ha sido para los intereses de la mayoría

y bueno pues a la vista de cuáles son los resultados de determinadas políticas

de modificaciones constitucionales de políticas presupuestarias etcétera obviamente la posición de un partido político que tiene como objetivo

de la sociedad que no concuerdan con el modelo de sociedad que defendemos nos lleva a decir que este es el momento oportuno como para cambiar

de la constitución cómo se hace pues ya sabe usted cómo se hace se hace

tiene que ser así no hay otra solución liderando el gobierno de españa el partido socialista obrero español tiene que ser así no puede ser de otra forma introduciendo en la constitución esa reforma para garantizar

esas políticas de atención social que son las que definen las que han definido y las que siempre construimos

con la oposición de algunos de ustedes o de muchos de ustedes

y bienvenido sean pero efectivamente si alguien tiene interés en defender posiciones políticas de defensa de los servicios públicos y de las políticas sociales

construimos la educación pública construimos las pensiones hemos construido los derechos de los trabajadores hemos construido la negociación colectiva hemos construido los derechos de igualdad de las personas en fin hemos construido lo que se llama esta españa social que

de la reciente historia incluso fue líder en políticas sociales y en políticas públicas en la unión europea superando a veces a los países más avanzados que nos doblaban

momento de reflexión muy profunda porque creemos que estamos preparados para tomar la alternativa a un nefasto gobierno de la derecha en españa capitaneado por el señor rajoy este es el momento y obviamente yo se lo tengo que contar a ustedes porque

ayudar y apoyar a que esto sea así este es el momento no va a haber otro mejor por lo menos

habrá una alternativa bien preparada que la vamos a ultimar este fin de semana en madrid y al que yo les invito a todos ustedes a que hagan apología de forma entusiasta muchas gracias

dígame si conoce una sola comunidad solo

tanto esfuerzo como euskadi para mantener el modelo vasco de protección social la sanidad y la educación dígame una y dígame una que además de hacer ese esfuerzo está cumpliendo con lo que se

desde ahí le escucho ninguna y yo creo que eso hay que poner en valor por lo tanto

mientras siga diciendo que somos recortadores sociales señor damborenea decía no sé

y juzgue usted haga una reflexión de esas silenciosas profundas con usted mismo

y reitera su compromiso con la unión europea de verdad de verdad

va a cumplir en el dos mil dieciséis por cuánto valor van a tener que hacer los ajustes le emplazo a que volvamos a hablar de esto después de las elecciones el primer trimestre del dos mil dieciséis le emplazo señor damborenea entonces tendremos los datos encima de la mesa sabe usted de qué les ha alertado la comisión europea

bildu en el parlamento vasco le ha cogido mucha afición al corta pega que los dos primeros párrafos de la iniciativa que han presentado son corta pega

que igual se puede concluir de ese hecho que no tienen arte escribiendo ekonomia

eustatek emandako datua en el dos mil trece el gobierno vasco tiene un déficit de setecientos cincuenta millónes para poder financiar el modelo vasco de protección social la sanidad y la educación

que usted juzgue que concluya cuál de las dos cuestiones es más significativa

y le voy a leer además las cosas que ustedes dicen en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria tendrá que hacerse

dicen ustedes también los ingresos no finalistas que se obtengan por encima de lo previsto no podrán financiar nuevos gastos

íntegramente a reducir la deuda viva o a evitar nuevas operaciones de endeudamiento dicen también

este se destinará íntegramente a reducir la deuda viva o a evitar nuevas operaciones de endeudamiento y para terminar

sí gracias presidenta el pasado día veinte de julio pero no este año sino del año dos mil nueve

registraba una iniciativa parlamentaria para solicitar al departamento de cultura del gobierno de entonces el desarrollo de un plan integral de promoción de la lectura dirigido especialmente a los escolares y que además pudiera fomentar una conciencia social sobre la importancia

iniciativa debatida el día dieciséis de noviembre de dos mil nueve se alcanzó un amplio acuerdo en aquella comisión y se firmó la siguiente transaccional el parlamento vasco insta al gobierno a que continúe desarrollando acciones de fomento de la lectura y desarrolle en colaboración con entidades e instituciones con competencias en este campo

una conciencia social sobre la importancia de la lectura en todos los ámbitos de la sociedad el plan de fomento de la lectura fue presentado durante

de dos mil doce en la sede del parlamento vasco en la correspondiente comisión se consideró el plan como un plan de nueva generación

que transforma la inteligencia en innovación y generación de conocimiento el plan de fomento de la lectura que conseguimos que el gobierno vasco pusiera

a través de aquella modesta iniciativa se estructuraba en veintitrés proyectos para dar respuesta desde la práctica a objetivos como mejorar las competencias de lectura y escritura

para situar a la lectura entre las prioridades educativas y culturales de la sociedad la consejera de entonces la señora urgell subrayaba entonces que el plan

contempla el hábito de leer como una herramienta para crear empleo y subrayó que la inteligencia es la materia

lo que justificaba que el plan defina la lectura como instrumento para ejercitar la inteligencia para convertirla en innovación y para traducir esa innovación

y progreso asimismo en la comisión de cultura tanto la consejera como el viceconsejero el señor rivera explicaron que entre los puntos principales de la iniciativa se pretendía que la lectura fuera una de las prioridades educativas y culturales de la sociedad cosa que creo que todos compartimos a día de hoy

enfatizaba la importancia de una iniciativa que de manera explícita y decidida no solo

sino que ladefine como factor estratégico de crecimiento incluso en el ámbito económico y laboral así como de vertebración y enriquecimiento social

solo será posible en la formación de ciudadanos independientes

creativos y comprometidos abiertos permanentemente al conocimiento interesados por cuanto a su alrededor acontece capaces de entender y adoptar

y dotados de un verdadero compromiso social ya que en todo ello la lectura nos brinda un auxilio imprescindible el señor basanta destacó

o el valor que se le concedía a la mejora de las bibliotecas escolares el plan se estructuraba en veintitrés proyectos que pretendían dar respuesta

objetivos uno mejorar las competencias de lectura y escritura de la ciudadanía vasca mejorar los índices de lectura

y situar la lectura entre las prioridades educativas y culturales de la sociedad a finales de la pasada legislatura estaban puestos en marcha una serie de proyectos el estudio sobre servicios bibliotecarios para el siglo veintiuno con treinta expertos y dos mil encuestas como base para elaborar

la red pública el desarrollo de una herramienta en línea para la actualización y mejora del mapa de lectura pública campañas de lectura en empresas creación de un espacio web

de salud publicaciones guías de lectura digitalización de fondos locales de las bibliotecas públicas municipales con coordinación con liburuklik

de euskadi o la creación de un servicio de apoyo a clubes de lectura y tertulias literarias dialógicas el pasado día diecisiete de febrero de dos mil quince digamos que quisimos saber exactamente qué era lo que este gobierno estaba haciendo en relación a todas estas cuestiones

recibíamos respuesta de este gobierno a una serie de preguntas realizadas por este grupo la consejera de educación política lingüística y cultura nos respondió de manera excesivamente parca a nuestro entender a un asunto que aunque no sea mediático consideramos muy relevante la señora consejera explicaba en aquella respuesta una serie de actuaciones que estaban llevando a cabo

y aunque efectivamente casi todas esas medidas o todas esas medidas consideramos que son absolutamente imprescindibles y todas ellas muy interesantes lo que se pretendía con esta iniciativa

tratar de terminar los trabajos impulsados por el gobierno anterior y poner en marcha todas las actuaciones que sean necesarias para fomentar la lectura en euskadi yo creo que en esta cuestión aunque no es una cuestión digamos mediática creo que es una cuestión relevante

es poco y por lo tanto es bueno que cada cierto tiempo estos asuntos puedan ser debatidos en este parlamento

y que el grupo que sostiene al gobierno pues que tampoco se ofenda por ello quiero decir que siempre hay cosas por hacer y por lo tanto el objetivo de esta iniciativa es decir al gobierno lo que se hizo

a partir de una iniciativa modesta de upyd quedan cosas pendientes por hacer algunas de esas cosas se están llevando a cabo durante esta legislatura pero hay muchas más cosas que tienen que hacerse a parte de terminar los trabajos iniciados por este propio gobierno

iniciativa se trata ya digo de animar al gobierno a no olvidar esta cuestión quizás poco mediática pero sí muy relevante de ahí nuestra iniciativa y de ahí la transaccional que hemos firmado con el único grupo que

qué es lo que dice esta transaccional proponemos instar al gobierno vasco a dar continuidad y completar las acciones iniciadas por el pasado gobierno vasco incluidas en el plan de lectura del país vasco aprobado la pasada legislatura dirigidos al impulso de la lectura y al fomento de una conciencia social sobre su importancia

durante la actual legislatura y a poner en marcha todas las nuevas iniciativas que sean necesarias para el logro de esos objetivos también pedimos al gobierno comparezca en la comisión correspondiente para que explique todas estas iniciativas que está poniendo en marcha que está llevando a cabo durante los últimos meses así como su incidencia presupuestaria y el calendario aproximado de aplicación creo que es una iniciativa más que razonable

muy interesante aunque sea poco mediática creo que es una de esas iniciativas que debería aprobarse por unanimidad es una iniciativa

que pretende controlar al gobierno ponerle deberes hacer un seguimiento en relación a lo que hace y tratar de dar nuevos pasos creo que sería interesante que se aprobara por unanimidad para que también se visualice que los setenta y cinco parlamentarios de este parlamento estamos a favor de que se impulse

entre la ciudadanía vasca ese simple hecho de que se apruebe por unanimidad ya sería positivo ya sería algo muy a tener en cuenta lo cierto es que upyd

pero creo que esta iniciativa en concreto puede ser una de ellas la presentamos con voluntad constructiva y para que pueda salir adelante
y para que podamos seguir controlando al gobierno muchas gracias al grupo socialista por firmar la transaccional eskerrik asko

el hecho de que hayan pasado tres largos años desde la presentación de dicho plan que haya habido un cambio de gobierno otros responsables en los asuntos culturales y educativos

pero factible nos da alguna que otra señal de alarma es cierto que las distintas administraciones han proclamado la necesidad de fomentar la lectura

no son del todo esperanzadores al menos para aquellos que creemos que la lectura nos proporciona un placer único que es el de trasladarnos por mundos que de otra manera apenas vislumbraríamos el mal es antiguo

de la escasa pasión de los jóvenes romanos por la lectura uno de los grandes problemas de la sociedad es que cada vez

diferencias entre ricos y pobres como las hay entre cultos y no cultos

una hoja a no ser que sea de un diario deportivo pero pocos se han puesto a pensar que la brecha cultural será la larga más importante que la brecha económica

de todos los ciudadanos a la hora de imaginar reflexionar y tomar decisiones gainera ekidin daiteke canadan argitaratutako

la lectura enseña muchas cosas algunas buenas y otras malas los buenos libros dan respuestas a preguntas que

la lectura nos libera y de alguna manera nos ata a lo que hemos sido y no queremos dejar de ser hay libros que nos transmiten la sensación de límite

las de infinito diseñar políticas para el libro y la lectura

no perder de vista el objetivo de la política y significa además

significa priorizar porque los recursos de la administración son limitados habría que repartir los recursos intentando favorecer a los que menos tienen a quienes cuentan con menos equipamientos culturales bibliotecas impulsar políticas en barrios

apenas tienen peso cultural aunque sí social no es lo mismo hablando de una política de lectura dirigida desde el centro koldo mitxelena que desde la casa de cultura de intxaurrondo asimismo es preciso diseñar políticas de fomento del euskara en los barrios alejados del centro

no es tan alta por otra parte es necesario impulsar la participación de los autores en el fomento de la lectura los escritores vascos euskaldunes o no son bastante accesibles orillando el tema lingüístico considerando a los escritores como son

en una política no sectaria y apartidista para que nos entendamos se trata de crear cadenas que unan a los autores con los lectores

con la ayuda de la asociación de escritores vascos se vienen organizando visitas de los escritores a centros de enseñanza extender dicha fórmula a casas de cultura

aunque persista el déficit de bibliotecas cada una de las existentes debe funcionar íntegramente cien bibliotecas mal gestionadas y pobremente surtidas sirven para incrementar el índice de bibliotecas por habitante sí pero no para transformar el comportamiento lector de la población pertsonen kalitatea bezalako gauza

toda política de fomento de la lectura tiene que partir de la idea de que fomentar la lectura es fomentar la democracia

adquiere autonomía se hace más dueño de su vida en una sociedad con buenos niveles de lectura se respeta y propicia la autonomía la diversidad y la pluralidad que no quiere decir la proliferación de voces diferentes sino que haya diálogo entre dichas voces toda política de fomento de la lectura trae consigo una política de fomento de la edición y requiere además el cuidado de los autores y que puedan dedicarse dignamente

esta es la aportación que hemos querido hacer a esta proposición no de ley que debatimos esta nuestra reflexión que pretende

para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan disfrutar de poesía con aresti celaya o felipe juaristi que viajen a mundos narrados por sarrionaindia

y cómo no que disfruten de la universalidad de la lectura con cervantes pío baroja

porque esto último conllevará a que vivimos en una sociedad trilingüe gracias al esfuerzo

en nuestro caso porque de la lectura se alcanza el rigor y el rigor

nos lo exigen en nuestras funciones parlamentarias como titulares de derechos políticos que son esos ciudadanos a los que les ofrecemos el fomento de la lectura recordando la definición de ciudadanos que obtendríamos leyendo a los sabios griegos

de las ciudades antiguas eskerrik asko eskerrik asko

decir que la iniciativa que el grupo upyd ha presentado o

turno como se ha dicho tiene su origen en aquella

que después el plan fue presentado el año dos mil doce y que

por parte de upyd porque en definitiva lo que se pide es continuar con el desarrollo del plan y evaluar el plan y nos parece lógico

por parte del gobierno evaluar nos parece prudente que después de tres años se evalúe se vea cuáles de esos objetivos generales

o líneas de actuación cuáles funcionan cuáles no cuáles se pueden aplicar cuáles no

además de los veintisiete proyectos que también contenía el plan un plan integral con seis ejes que nos parecen importantes y que definen de alguna manera lo que es el conjunto del plan leer para aprender leer para innovar

leer para crear leer para compartir y leer para convivir que decía el viceconsejero que presentó el plan en aquel momento junto con la consejera nosotros compartimos la enmienda de transacción que se ha hecho

del hábito de la lectura de promocionar la lectura y de la importancia que tiene la lectura en todos los órdenes de la sociedad y para todos los colectivos por lo tanto

y como decía el señor maneiro esperemos que sea aprobada por unanimidad nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

la lectura no es solamente una competencia cultural vinculada al enriquecimiento y desarrollo personal

es por lo tanto un instrumento fundamental en el desarrollo personal social y económico de un país el desarrollo de la competencia lectora de múltiples factores entre los que caben destacar la familia la escuela

es por ello que el gobierno vasco está impulsando y coordinando las actuaciones de fomento de la lectura en el ámbito escolar

cumpliendo de un modo más que razonable con los grandes objetivos del plan de fomento de la lectura y con nuevos instrumentos que mejoran el diseño del propio plan como son entre otros la ley de aprendizaje a lo largo de la vida y eliburutegia les hago una pregunta en base a unas afirmaciones que han realizado ustedes aquí

o que no se evalúa el plan acaso han preguntado al respecto no hace falta creo yo una pnl para preguntarle al gobierno a ver lo que está haciendo si es que realmente se quiere saber qué es lo que se está haciendo

ya sea respecto al desarrollo del plan ya sea respecto a su evaluación

nos encontramos con una propuesta de transacción que lo único que hace es dar por buena la ocurrencia del señor maneiro

ahora nos encontramos debatiendo una iniciativa que se plantea en base a una repuesta de gobierno en febrero

con el argumento ciertamente objetivo y contundente de que las acciones llevadas a cabo por el ejecutivo actual no son lo suficientemente ambiciosas como se puede ver es un argumento incontestable basado en un riguroso análisis de las actuaciones del gobierno

se nos trae hoy nueve meses después lo cual ahonda todavía más en el rigor del argumento del señor maneiro para justificarla visto lo que ha pasado hasta ahora con las anteriores intervinientes qué estamos repitiendo el dato de abril de dos mil doce para qué lo estamos repitiendo

responderé con otro argumento incontestable para rechazar la propuesta y es que el gobierno está actuando de un modo adecuado con esto podría terminar pero no me resisto a decir que vista la trayectoria de la propuesta

nos encontramos ante una actuación totalmente prescindible que no aporta absolutamente nada al fomento de la lectura y que hay que encuadrarla en la estrategia del señor maneiro

presentándolas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero convergiendo

esto a nosotros nos parece un fraude parlamentario por lo que votaremos en contra de la proposición y mientras tanto seguiremos con el fomento de la lectura actuando con el debido rigor eskerrik asko

de ocariz por su apoyo a esta más que razonable iniciativa y gracias por los argumentos que ustedes han añadido a esta idea que creo que ya digo es perfectamente razonable más allá de que eh bildu y el partido nacionalista vasco

la hayan tildado de ocurrencia vamos a ver el año dos mil nueve se presenta una iniciativa por parte de upyd para pedir al gobierno de entonces que presente

de la lectura efectivamente tres años después casi tres años después conseguimos entre todos los grupos que el gobierno presente ese plan y a partir de la presentación de ese plan se ponen en marcha una serie de iniciativas que creo que han tenido incidencia positiva en el conjunto de la sociedad una vez que han pasado tres años es decir no al mes siguiente no a los seis meses sino una vez que han pasado tres años consideramos adecuado volver a traer este asunto volver a decir al gobierno vasco oigan sigan en la línea iniciada por el gobierno anterior porque en este asunto hay muchas cosas que pueden mejorarse

ustedes que en este campo está ya todo hecho no hay nada que mejorar consideran ustedes que todos nosotros leemos suficiente consideran ustedes que los jóvenes vascos los escolares etcétera

consideran ustedes que todos los objetivos planteados en ese plan han sido ya alcanzados consideran ustedes que todo el trabajo está ya perfectamente realizado nosotros pensamos que no que efectivamente siempre hay cosas que hacer por un lado

que el gobierno vasco está tomando determinadas medidas pero evidentemente siempre hay margen para la mejora

en fin tampoco me voy a pelear con ustedes en relación a esta cuestión pienso que es algo de sentido común la señora breñas no le ve sentido

de la legislatura más allá de que todavía falte un año y considera que esta es una iniciativa que presenta upyd para tener protagonismo

pero en fin si considera que usted presentamos esta iniciativa para obtener protagonismo en fin usted misma el señor arieta la califica de ocurrencia y dice algo que

considera que la defensa del fomento de la lectura es una de las grandes obsesiones de la legislatura de upyd es la primera iniciativa que presentamos la última legislatura la segunda en seis años pero usted considera que es una de las grandes obsesiones de

y que es un fraude parlamentario pedir al gobierno que fomente y que ponga en marcha nuevas iniciativas para el fomento de la lectura considera que es un fraude parlamentario ciertamente yo pensaba que esta iniciativa iba a ser aprobada sin mayor problema hasta que me dijeron creo que es el señor arieta quien defiende este asunto en el parlamento vasco y digo

unanimidad señor arieta no sea usted tan sectario no sea usted tan sectario

que es una iniciativa para el fomento de la lectura que es una iniciativa en positivo para animar al gobierno que siga tomando acciones a que siga haciendo lo que está haciendo y

en qué no está de acuerdo con esta iniciativa señor arieta dar continuidad y completar las acciones iniciadas por el pasado gobierno

y poner en marcha todas las nuevas iniciativas que sean necesarias para el logro de esos objetivos y que además pueda comparecer la señora consejera en la comisión para que explique todas estas actuaciones hombre yo no creo que esta sea una iniciativa

que pueda ser tratada de esa forma pero en fin usted mismo señor arieta creo que es una iniciativa razonable en positivo no pretendía ganar protagonismo al presentar esta iniciativa pensaba que iba a haber unanimidad

en todo caso lo que primero haremos será pedir la comparecencia de la consejera para que todas estas actuaciones que está llevando a cabo puedan ser explicadas y nos explique también qué otras actuaciones va a poner en marcha creo que

una buena vacuna contra el sectarismo es leer más

lea más leamos todos más en castellano en euskera y en inglés no importa en absoluto en qué idioma se lea

no tiene relevancia no importa lo que importa es el contenido y en este caso

en este objetivo que yo pensaba que era compartido pero que

casualmente por las formaciones nacionalistas gracias eskerrik asko maneiro jauna azkue jauna zurea da hitza

egun on berriro por una parte me alegro que se discuta y se debata

la importancia a la lectura entre y me alegra también el tener el que todos los grupos

y que conllevaba una estrategia e ideas del plan de lectura del país vasco un mapa estratégico

de lectura del país vasco mantenida lógicamente y mantiene tres oportunidades

estamos de acuerdo en eso estaremos de acuerdo en seguir lógicamente con el plan pero hay un tema que me ha hecho salir si no lo hubiese dicho y es el

a la evaluación en política negarnos a la evaluación es negarnos a la política

o mal las cosas la verdad deténganse de nuevo en la lectura de lo que se solicita en la enmienda
porque evaluar es ser demócrata eskerrik asko azkue jauna

ni la pnl ni la transacción sirven para nada que el gobierno no esté ya haciendo

otra cuestión es la estrategia del señor maneiro

las acciones iniciadas por el anterior gobierno mire no en vano

vuelvo a preguntar en qué datos se basan para decir que no se está completando el desarrollo del plan

en qué se basan para decir que no se está evaluando ustedes entienden que solo valdría

las veintitrés propuestas en su literalidad pretenden como el señor maneiro poner el acento en la literalidad de los veintitrés proyectos en vez de en los objetivos del plan acaso no han pasado tres años acaso los planes no se van a actualizando y adecuándolos a la realidad del momento evaluación señores evaluación y más si se mantienen sus objetivos no han pedido ustedes hoy mismo aquí y el señor azkue acaba de salir exclusivamente para esto la evaluación del plan

creen que está haciendo el gobierno y por qué creen que está actuando como está actuando pero eso es lo que al señor maneiro le parece mal

lo que pasa que luego ya vemos por qué ha traído la iniciativa del fondo nada de nada mire señor maneiro usted

nos ha quedado claro a lo largo de sus intervenciones en este parlamento es que usted y hablando de leer

que para usted son el todo la verdad rebelada prácticamente mire me va a permitir que le recomiende ampliar sus lecturas a otros autores para que entienda qué es la democracia

usted se muestra a sí mismo como la cabeza pensante y el guardián de la sociedad

de mentirosos y patrañeros y defender el pensamiento único a todo el resto de los grupos de la cámara a todos todavía hace unos poquitos días aquí usted en qué ideología encuadra usted esta actitud

saben perfectamente lo que botan porque están precisamente preparados porque leen cosas diferente a las que usted aconseja

del fomento de la lectura y en contra de la estrategia de manipulación suya señor maneiro porque votaremos en contra de la transacción que se justifica en una aserto falso

de evaluación del plan de fomento de la lectura es justo lo contrario eskerrik asko